se han sufrido los efectos del paso de diversos temporales que por su insistencia

por eso queremos ocuparnos hoy durante unos minutos de lo mismo que se han estado ocupando todos los vascos y vascas en las últimas semanas de los diversos temporales que nos han azotado y de sus consecuencias la más dramática de todas la muerte de un joven senegalés en ondarroa por lo cual aprovecho la ocasión para recordarle nuestro apoyo y solidaridad a sus allegados nuestra intención es sumarnos desde el parlamento a los esfuerzos que hemos constatado se están haciendo desde las distintas instituciones concernidas queremos que en las instituciones tengan en cuenta

en el momento de la toma de decisiones pronunciamientos de este tipo no son nuevos

se produjo la virulenta ciclogénesis explosiva de febrero de dos mil diez también se activaron mecanismos de coordinación desde el departamento dirigido

con la diputación de álava el territorio más afectado así como con los representantes municipales y los de la administración del estado entonces como hacemos ahora este parlamento consideró oportuno reforzar esa actuación y me remitiré a lo que dijo el proponente del partido nacionalista vasco en ese debate de dos mil diez

creemos haber aportado la posibilidad que puntos suspensivos cualquier ayuda complementaria que surja de las instituciones vascas no tengan ningún problema de incorporarse para dar cobertura a este problema a las personas y a las instituciones afectadas

el gobierno vasco actuó con celeridad en la búsqueda de soluciones urgentes ante situaciones imprevisibles entendemos que a eso se ha dedicado también el actual ejecutivo tampoco dedicaremos tiempo a reprochar que no haya un marco legal propio en este asunto porque hay una previsión de traer una ley de emergencias según el calendario legislativo como por cierto tenía el anterior gobierno que incluso lo trajo

se paralizó su tramitación por las habituales cuitas competenciales y después decayó por fin del periodo de sesiones esperamos

que en este caso como está en este semestre como está comprometido el gobierno

conociendo como conoce que la comisión arbitral no puso pegas al proyecto elaborado por el gobierno socialista

en el pleno desarrollo de nuestras herramientas de gobierno en que no se rompa la línea de coordinación mostrada hasta la fecha en el desarrollo legislativo que mejore estas funciones en el futuro

medidas complementarias a las compensaciones económicas legalmente establecidas hablamos más allá de la reparación de infraestructuras de la posibilidad de habilitar

preferente para colectivos afectados hablamos de hosteleros afectados que deben realizar obras de mejora que tal vez en su totalidad no estén cubiertas por los seguros

que no solo han sufrido daños en su infraestructuras sino que alguno de ellos no han podido salir a la mar

es cierto que estos temporales han coincidido con la parada biológica de la flota de bajura pero las embarcaciones de artes menores las que realizan su faena en el día a día han estado casi mes y medio sin salir y por tanto sin ingresos aunque ellos sí han tenido que seguir haciendo frente a sus cuotas de autónomos y demás

existen instrumentos económicos planes habilitados al respecto con disponibilidad presupuestaria que pueden ser analizados por el gobierno y que nos consta que ya existe partida ampliable que puede

en la dirección de emergencia del actual presupuesto dos mil catorce me estoy refiriendo con esta iniciativa

y antes de poner en marcha el calendario de actuaciones todo ello previsto según el gobierno vasco para la primera semana de marzo se tengan en cuenta las consideraciones de este parlamento por lo que espero que lo mismo que

la unanimidad de esta cámara al respecto sea

la misma que el parlamento se pronuncie de manera unánime al respecto en este sentido agradezco

el haber podido llegar a un acuerdo en el que se recoge lo que ya había aprobado este

un añadido en el que nos referimos como he dicho a la consecuencia más dramática

de estos temporales como ha sido la muerte de un ciudadano senegalés en ondarroa

que han tenido que sufrir en sus bienes los efectos de estos temporales

ez dakit hitzez hitz jaso deten pero queremos que las instituciones tengan en cuenta

y me parece correcto que las instituciones tengan en cuenta lo que decide este parlamento pero querría decir que las instituciones aún antes de que este parlamento se haya pronunciado a este respecto están realmente implicadas desde el primer momento

a todas las consecuencias que han tenido los temporales de este primero de año

tal y como se va a aprobar en la enmienda de transacción se reconoce

un cierto y cierto liderato o liderazgo al gobierno vasco

todas las propuestas que se plantean yo creo que el gobierno desde el primer momento y públicamente y es de todos conocido

ha ejercido esa capacidad y ha convocado y ha mantenido reuniones y ha establecido un calendario de reuniones y no solamente eso sino que se ha comprometido también a plantear una programación

para que nuestra costa pueda responder a las necesidades que se planteen tanto desde el punto de vista de la utilización de las infraestructuras náuticas deportivas o pesqueras como desde el punto de vista del servicio de las playas para este verano

agradecerle la labor que está realizando su departamento en este sentido y sin más espero que toda la cámara

gracias señora presidenta buenos días señorías señor lehendakari consejeros

queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo a todos las personas afectadas por el temporal en el litoral de euskadi esta situación de ciclogénesis explosiva unida a las mareas vivas fue lo que en la pleamar de la madrugada del dos de febrero originó

entre siete y ocho metros que arrasó la costa y afectó seriamente a localidades pues como bakio bermeo zarautz san sebastián y otras la situación fue excepcional y todas

competentes así lo entendieron desde el primer momento y quiero felicitar a todas las administraciones competentes desde el día tres de febrero el gobierno de españa tiene en marcha un operativo para identificar daños valorarlos y priorizar las actuaciones que atendiendo al reparto competencial

con el resto de administraciones autonómicas forales y municipales para buscar

con una relación provisional con daños ocasionados los días uno y dos desde el gobierno de españa

paseos marítimos playas embarcaciones muelles diques de puerto comercios viviendas instalaciones ferroviarias y puertos de la ultima relación provisional de daños se calcula que la parte de reparación de daños que corresponde al estado en la costa del país vasco supera los diez millónes de euros

en gipuzkoa y el resto en bizkaia los daños en materia de costas en el conjunto del litoral

incluyendo infraestructuras públicas y privadas se eleva a ciento quince millónes de euros

y necesarias como prevención ante nuevos temporales y mayor seguridad reparación de diques escolleras reposición de arena en aquellas playas donde

el gobierno va a someter a aprobación mañana viernes un real decreto ley que incluirá todas las medidas a adoptar en el ámbito general de la administración del estado para paliar los daños

las solicitudes de modificación presupuestaria y la memoria necesaria para declarar las obras de emergencia por lo tanto ya está en marcha el inicio de las actuaciones que

y las actuaciones que tengan que ejecutar empresas privadas pues el proceso va a ser

en la adjudicación aunque sea por la vía de urgencia el viernes catorce tuvo lugar en el gobierno vasco la reunión de todas las administraciones competentes en esta materia

la buena disposición entre las partes y se acordó definir las actuaciones más urgentes entre todos teniendo en cuenta la información que proporcionen los ayuntamientos este martes según la consejera informó iban a

donde se volcará la información para que los equipos técnicos junto con los cuatro niveles de la administración

autonómica y estatal se defina el calendario y se detallen los daños y actuaciones y la prioridad creo que se está llevando con bastante rigor que las administraciones

ante una situación excepcional la actuación de las administraciones ha sido ágil rápida

como portavoz del grupo popular felicito a todas las administraciones que han intervenido o que están interviniendo en reparar los daños que este temporal ha

por lo tanto bueno pues creo que felicitamos a todas nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jauna

el sentido de la proposición que hemos traído y me congratulo de que parece que va a ser aprobada por

la transacción que hemos llegado con el partido nacionalista efectivamente partía de la constatación y lo he dicho en mi intervención de que se está actuando

básicamente animar reforzar y apoyar esa coordinación que creemos que es importante somos conscientes de que hay muchas competencias en juego y diversas administraciones que tienen esas competencias por lo que la coordinación es importante es muy importante no entrar en discusiones

de a quién le corresponde porque eso está bastante bien determinado sino

actuar en qué sentido en el sentido segundo de nuestra proposición que era complementar las ayudas y facilitar a las personas en definitiva

que es lo que más nos importa facilitar la recuperación de sus bienes de los bienes que han sido afectados por esto

sentido de que hayamos traído esto aquí coordinación sin entrar en disputas y sobre todo actuar para paliar a los afectados que es lo más importante

la gran refinería de petronor perteneciendo a repsol se sitúa entre la costa de zierbena y muskiz

zonas de valor natural y se ha ocupado la primera franja para la refinería y actividades logísticas

que invadiese la costa además sigue destruyéndose

durante los años de burbuja inmobiliaria incrementó anualmente superficie artificial

de los primeros quinientos metros está urbanizada

construcción a toda costa que se ha hecho también en nuestra costa es lo que ha traído la destrucción de gran parte de la costa eta uste dugu gogoeta hori

señorías buenos días bienvenidas también a las personas que han acudido a ver

moción en este parlamento esta moción que presento en nombre del grupo popular es consecuencia de la

referente al futuro de las escuelas de formación profesional agrarias y náutico pesqueras

decir que estos centros hoy están adscritos al departamento de educación y que sus trabajadores
ante el conocimiento de ser traspasados a otros departamento o entidad no dependiente de educación isiltasuna mesedez

están hartos de la trayectoria que están padeciendo han sufrido hasta cuatro traspasos diferentes en los últimos tres años y la señora consejera en la interpelación nos confirmaba que pretende mantener

en estos centros esta situación junto con la falta de recursos además de edificios en situación deplorable está suponiendo una merma

hecho que parece no preocupar a este gobierno si el eje sobre el que debe pivotar la enseñanza es el alumno

es una máxima para el sector educativo para el departamento de desarrollo económico y competitividad el alumno es el gran olvidado no

en la mesa negociadora de veintiocho de junio en la que participaban el departamento de educación y departamento de desarrollo económico perdón

hechos cuando este gobierno toma posesión se encuentra con la formación reglada y continua náutico pesquera y agraria en educación

al publicar el decreto de estructura del departamento de desarrollo económico y competitividad incluye en él la formación agraria y náutico pesquera dentro de la dirección de desarrollo rural y litoral y políticas europeas no dice nada de la formación reglada

sí especifica la promoción de la capacitación profesional en materia agraria pesquera y del medio rural e impulso de forma coordinada con otras instituciones y agentes implicados

hecho es el que empieza a levantar las alarmas cuando ya estaban calmándose los ánimos del anterior cambio nuevamente la incertidumbre se instala en el ambiente

se firma un documento de propuesta de formalizar un acuerdo de encomienda de gestión para que el personal docente y no docente del departamento de educación

imparta la formación agraria y náutico pesquera y demás actividades complementarias en las escuelas adscritas al departamento de desarrollo económico y competitividad bueno

no del todo porque al menos el personal permanece en educación y se garantiza su estabilidad

por el viceconsejero de agricultura se expone que la intención de informar al personal de los pormenores del traspaso

debido a las consultas que han hecho a los servicios jurídicos el planteamiento es que el personal docente dependa del departamento de educación no se va a

ni personal el personal se regulará a través de la encomienda de gestión surgiendo un órgano de coordinación

las concreciones de esta encomienda de gestión las remiten a la mesa técnica que se convocará próximamente mesa que nunca se convocó y que pasan los meses hasta que en el mes de enero el gobierno presenta un informe de la viceconsejería de régimen jurídico donde concluye que no corresponde a educación el personal de los centros

porque la competencia es de agricultura sorprende en este informe

que en ningún momento hace mención a la formación reglada nos parece muy destacable este aspecto y no sé si es más importante por lo que dice que por lo que omite

no haga referencia y diferencie entre formación reglada y formación continua entre formación pública y formación privada señorías la formación reglada

nunca ha sido una competencia de agricultura y por ejemplo tenemos la orden que

para autorizar a agricultura que imparta un curso y le dice el otorgamiento de la autorización contenida en la presente orden

no implica en modo alguno la obtención de ayudas a través del régimen de conciertos económicos y además dice el centro deberá adaptarse en cuanto al número de puestos escolares y relación máxima profesor alumno por unidad escolar titulación y especialización del profesorado

hecho que nunca ha cumplido agricultura porque agricultura nunca ha dado formación profesional pública nunca la ha dado señorías se pueden preguntar cuál es la diferencia entre estar en educación o estar en otro departamento administración o entidad privada

los centros que no son gestionados directamente por este departamento son centros privados gestionados con dinero público en educación el centro mantiene total independencia a cambio de sus intereses políticos en otro departamento en otra administración están

dependiendo de quién mande en cada momento y cómo quiera

en cuatro años los centros de educación profesional

en cuatro organismos mendikoi itsasmendikoi

años esto es estable esto qué genera esto es no tener ningún interés lo que ha movido aquí es el interés político

el alumno en definitiva como les decía en educación los centros están perfectamente organizados y estructurados en agricultura no hay estructura no existe

de cada cambio político son los que determinan de una manera oculta

educación tiene normativa para todos los institutos de formación secundaria agricultura carece de normativa ni general ni específica para centros de formación no tiene

esta figura en las rpt de profesor laboral docente en educación existe procedimiento legal público y transparente para seleccionar y baremar al personal candidato a sustituciones y bolsas de trabajo en agricultura cómo se hace las bolsas de trabajo qué criterios utilizan dónde está la transparencia

nueva paralela a la que tiene educación para solventar todas estas cuestiones pero señorías no quedaron ustedes la semana pasada

ustedes se contradicen permanentemente en qué quedamos o tal vez

a que sean otras administraciones las que deban reducir la estructura hoy la formación continúa que se imparte en las escuelas agrarias es competencia de hazi y todos los gastos corrientes incluso las comidas de algunos trabajadores de hazi se paga con el presupuesto que educación destina para formación reglada

señorías qué estamos haciendo pero qué estamos haciendo lo triste es que a día de hoy no hemos oído ni una

y la pregunta es señorías por qué educación no

educación como responsable de la formación profesional pública no dice nada

qué pasa aquí señorías entendemos que esto es

hacer una formación profesional pública para el sector primario para el sector náutico pesquero cómo es posible que el departamento

a día de hoy no se haya pronunciado no haya hablado con sus profesores que están en su departamento para agricultura ya sabemos que el alumno no existe ya les decía les da exactamente igual la experiencia en estos dos cursos en la formación agraria y náutico pesquera en educación ha sido muy positiva

en la autonomía de gestión de los centros señorías hay cosas que están pasando que no deben de pasar porque mire la formación profesional náutico pesquera si estos centros dejan educación

que pertenece a educación que solo oferta una parte muy pequeña que es acuicultura un claro agravio a la demanda formativa del entorno la flota necesita titulados náuticos pesqueros en las especialidades de puente y maquinas el alumnado quedaría

y como consecuencia los alumnos ni siquiera tendrían la opción alternativa de presentarse a las pruebas libres para la obtención de títulos de técnico y técnico superior como sí lo pueden hacer de las escuelas profesionales públicas eso no se puede hacer

no se puede hacer y esto señorías es una grave discriminación

señorías a los centros náuticos pesqueros vienen alumnos de otras comunidades autónomas porque aquí se conceden los títulos de manera pues mucho más fácil además señorías

sin enterarse de nada lógicamente con la mera asistencia han recibido los certificados esto debe ser lo que nos da prestigio lo que es tan importante porque señorías

aparezca alguien le pongan el nombre y se lo lleven mucho más rápido mucho más económico señorías

al que tanto apela el partido nacionalista señorías nosotros

cuatro cosas que nos parecen importantes situar la formación agraria y náutico pesquera en el departamento de educación

realizando las modificaciones legales que resulten necesarias segundo aprobar en el plazo de seis meses el decreto de centros integrados de formación profesional

en el directorio de centros públicos de formación profesional con su carácter específico de centros integrados asegurando la financiación de la formación específica

recualificación agraria a través de los fondos previstos para tales efectos respetar y cumplir los compromisos adquirido en junio de dos mil trece

garantizando al personal sus derechos laborales y de negociación colectiva sin menoscabo alguno y cuarto proceder a abordar de manera urgente las obras que aseguren

en el instituto politécnico marítimo pesquero de pasajes

los últimos dos años en una situación deplorable y la verdad es que requiere urgentemente de unas obras de acondicionamiento

el gobierno no ha presupuestado una cantidad y por qué va tan lento en la tramitación para poder abordar estas obras
con celeridad nada más muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta consejera señorías buenos días bienvenidos también a los representantes del personal

miren el catorce de mayo del pasado año en la comisión de desarrollo económico y competitividad se aprobó una iniciativa socialista por la que se instaba al gobierno vasco a volver a situar la formación agraria y náutico pesquera que se impartía en las escuelas de

en el departamento de educación política lingüística y cultura reordenando así las competencias y con el objetivo de mantener en euskadi una formación profesional fuerte

un sistema integrado de formación profesional transformando las escuelas de formación agraria y náutico pesqueras

integrados de formación profesional los socialistas entendemos que esta formación que la formación profesional es y debe ser la columna vertebral del sector público y estamos convencidos de que el sector público de educación es la mejor garantía para preservar la educación y la formación todo ello como un servicio público

con su carácter específico de centros integrados inserta estos centros en esa columna vertebral del sector público que representa el sistema educativo

y además al convertirse en centros integrados se permite ofrecer y se prestan de hecho otros servicios como la formación para el empleo la transformación de las cinco escuelas

aún más la vinculación del sector agrario y el náutico pesquero con los centros formativos y los servicios que en ellos se prestan

un máximo órgano de gobierno el consejo social un órgano en el que están representados productores miembros de organizaciones empresariales y sindicales representativas todas ellas del sector y no estamos proponiendo algo fuera de lugar ninguna ocurrencia descabellada porque otros centros de similares características y pertenecientes también

llevan años vinculadas y perteneciendoal sistema educativo vasco perteneciendo al departamento de educación y me refiero

a la escuela de agricultura de mutriku y a la escuela técnica superior de náutica y máquinas navales

y consideramos que la permanencia a la vinculación en educación de las escuelas de arkaute fraisoro derio bermeo y pasajes permite una mejora en la gestión de los centros

han comentado los anteriores portavoces una mejora tanto académica

porque si la gestión del centro la realiza el departamento de educación depende del departamento de educación la gestión y el funcionamiento del propio centro desde los órganos de dirección hasta el propio personal docente y no docente y la propia información impartida

normas democráticas transparentes y lo fundamental iguales para todos estos criterios del departamento de educación tienen como objetivo la ordenación la optimización y la coordinación de la oferta formativa bajo el punto de vista académico y de mejora de la calidad de la enseñanza

ciertas costumbres y métodos de funcionamiento para nada aconsejables en los tiempos en que vivimos y en pleno siglo veintiuno por eso el partido socialista está satisfecho con la enmienda que hemos logrado transaccionar porque esta enmienda que ha comentado antes la portavoz del partido popular refleja absolutamente integral la iniciativa socialista que se aprobó en mayo del año dos mil trece y además supone el reflejo de lo que

nos han solicitado y han estado solicitando al departamento de desarrollo económico y competitividad y además supone esa transformación de los centros de las escuelas agrarias y náutico pesqueras en centros integrados de formación profesional

sumar un mayor consenso que la iniciativa aprobada en mayo del dos mil trece en esta cámara

hoy somos más y lamento que el pnv no pueda avenirse a esta transacción y hemos llegado a esta transacción porque entendemos que el departamento de educación

con inclusión de sus diversas etapas y niveles y también la educación superior y también aquellas actividades de aprendizaje que conlleven a adquisición o incremento de las cualificaciones

la inclusión en el sistema educativo de estos centros permite una definición de objetivos de líneas de actuación y también algo muy importante la valoración de los procesos y la valoración de los resultados yo soy muy consciente de que esta posición no es compartida por todo el mundo y por eso quisiera también agradecer a las catorce entidades vinculadas con organizaciones empresariales de pesca cofradías varias cooperativas

su interés en esta cuestión y el habernos hecho llegar su opinión al respecto una opinión que yo y mi grupo el grupo socialista respeta pero que no comparte

que desde educación no se puede y no se va a llegar a la especificidad agraria o náutico pesquera o es qué no se ha llegado a través de educación y de la formación profesional a la especificidad de la máquina herramienta de la industria de la sanidad o de la hostelería

en este mismo sentido que hoy vamos a lograr aprobar al menos mi grupo no recibió ni una sola opinión ni un solo correo al respecto pues bienvenidas sean las opiniones de esas entidades en el día de hoy

que tanto a esas entidades como a nosotros nos une un mismo objetivo tener en el sector primario tanto en lo que afecta a agricultura y ganadería como a la pesca y también en el sector marítimo y náuticos unos buenos profesionales

y cualificados y creo que es necesario que conozcan que los centros de enseñanza de euskadi que imparten los ciclos formativos de otras familias profesionales no se adjudican

en los diferentes departamentos del gobierno vasco en función de su denominación y de las políticas sectoriales que les competen

lo que realmente importa y lo que se prioriza es la voluntad y la posibilidad de realizar una gestión eficaz y excelente de la formación profesional se ubican en educación la singularidad insólita que se ha producido con los centros de formación profesional

a los departamentos de agricultura y pesca hasta el año dos mil doce

que es el de educación como ocurre de forma parcial aquí en el país vasco en toda españa y en europa y todavía hay algo más chocante y es el hecho de la falta de coherencia en la acción del gobierno respecto a otros centros

y que el gobierno vasco ni ha tenido ni tiene intención ni voluntad de incorporarlos al ámbito de gestión del departamento de desarrollo económico y competitividad

la formación profesional vasca es marca de país podemos estar orgullosos de nuestro sistema educativo y de nuestra formación profesional

es fruto de un esfuerzo compartido es hoy una formación prestigiosa y prestigiada

y que ha crecido desarrollando estrechos vínculos con nuestro tejido productivo y que ha tenido además la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas a los nuevos tiempos como ocurre con la innovación como con tknika y que no se excluye ni ha excluido ni excluirá esperemos

pesquera yo creo que la formación en general y la formación agraria náutico pesquera en este caso en particular deben experimentar mejoras continuas

con un sistema competencial propio con un sistema educativo propio con una formación profesional de calidad y prestigiosa
y debe ser parte de una columna vertebral del sector público vasco que representa el sistema educativo muchas gracias eskerrik asko corcuera

bienvenidos a todos los profesores de las escuelas agrarias

para continuar ilustrando sobre lo que el pasado día mi compañera de grupo garbiñe mendizabal nos mostró he de decirles que frisia

todas las tiene el estado eso sí para seguir ilustrándoles la formación agraria en sus diversas vertientes depende del ministerio de agricultura del estado

eta hala jarraitzea espero dut en la pasada legislatura

probablemente comenzó su andadura con muchas ideas y proyectos entre los que para nada

normalizar las cosas y normalizar a ciudadanas y ciudadanos no figuraba la formación profesional del sector primario se ve

normalizado sí es cierto que entre sus iniciales ideas

un supuesto entramado clientelar maléfico que el departamento de agricultura había edificado durante años aquel entramado era sencillamente una arquitectura institucional diseñada para mejor dar servicio en cualquier caso se pusieron manos a la obra en su obsesión

en tanto trabajaban para la reducción recibieron demandas sindicales de los trabajadores de formación agraria eso no me lo invento

de aquellas demandas sindicales se concluyó sin más en la transferencia de la formación agraria al departamento de educación

pues bien con objeto de atender demandas sindicales que no rechazo sin consultar con el sector agrario al respecto lo que sí rechazo

empresa pública hacia el departamento de educación el veintiuno de agosto de dos mil doce

anunció la convocatoria de elecciones en el último segundo

la sindicalización del conflicto y la falta de información y contraste con el sector agrario

el uno de agosto de dos mil doce el informe del director de la oficina de control económico del gobierno señala

la entidad de origen de dichos trabajadores sea la que pacta con su representación cuáles van a ser las condiciones en las que se producirá la nueva adscripción

que señala que garantiza los salarios consolidados en cada trabajador y un complemento personal en el caso de que la retribución correspondiente a la categoría asignada a la entidad de destino sea inferior a la que en hazi el veintitrés de julio de dos mil doce

esta dirección no considera adecuado que el personal mantenga unas condiciones ventajosas incluso aprobadas muy recientemente respecto a las que tiene el personal análogo del departamento de educación y es que como dice el informe antes de proceder a la transferencia se firmó un nuevo convenio deprisa y corriendo

de esta transferencia y como dijo séneca no puede haber orden cuando hay mucha prisa langileak eta beren ordezkari sindikalak lan baldintza hobeak lortzen saiatzen dira

podría decir que una información y atención a las diversas organizaciones agrarias

en este caso nada pero nada de nada exclusivamente se miró a la demanda de los trabajadores de los centros lo que me parece bien siempre que hubiera sido con equidad

lo que en aquel rifi rafe de urgencias para finalizar su operación antes de finiquitar la legislatura nadie se paró a mirar

la ley de política agraria alimentaria aprobada en diciembre del dos mil ocho la citada ley dice en su artículo setenta este ámbito formativo comprende la formación reglada no universitaria y la continua y se desarrollará directamente por el citado departamento o por otras entidades que no departamentos previo acuerdo del consejo de gobierno y sigue la oferta formativa ligada a este ámbito se diseñará en coherencia con la contemplada en el sistema educativo vasco

las leyes las aprueba este parlamento para cumplirlas y en eso está el departamento de desarrollo económico y competitividad lege horien arabera jaurlaritzako nekazal eskumena duen

alegia hezkuntza sailarekin elkarlanean jardun dezala sabedores en el gobierno de que los trabajadores de los centros están siendo mareados con tanto cambio lo que sin genera lógica inquietud se ha venido trabajando durante un año en intentar mantenerlos en su actual ubicación el departamento de educación y dirigir la formación

pues se cumplía la ley en los términos de mantener la responsabilidad en agricultura y se garantizaba la coherencia con educación el mes de enero un informe jurídico laminó aquella posibilidad

de reversión del personal a su departamento porque nosotros atendemos los informes en ese sentido de acuerdo con lo inicialmente propuesto con la moción del pp hemos entendido correcto el hecho de que las escuelas agrarias y marítimas pesqueras se incluyan en el futuro decreto de centros integrados

en definitiva el partido socialista sin tenerlo previsto y sin hablar para nada del asunto con las organizaciones agrarias y atendiendo exclusivamente a los sindicatos de trabajadores de las escuelas

al borde de la irregularidad y saltándose la ley de política agraria lo que al final ha provocado una inestabilidad en las escuelas y en los trabajadores

encontrándose con problemas jurídicos que al menos hoy parecen imposibles de resolver

toda la vida había pasado desapercibido ahora resulta ser de trascendente importancia entendemos o así lo hemos plasmado en nuestra enmienda que una vez visto el decreto de centros integrados sea el propio departamento de desarrollo económico que aquí venga a presentar a los grupos

de organización no ha sido el pnv ni sus gobiernos quienes movieron la formación agraria contra la ley provocando como consecuencia una enorme inestabilidad en un subsistema público

que por razonables que fueran han dejado al margen los intereses sectoriales

para pretender un desamarre contra la ley con inciertas conclusiones y todo con prisas para terminar

probablemente porque escucharon a marañón don gregorio que dijo la rapidez que es una virtud

a todas y a todos señores consejeros compartimos los argumentos que se han expuesto por parte de los grupos que han firmado esta transaccional

lo haremos compartimos cada uno de los puntos que se proponen ya votamos cosa semejante en mayo del año dos mil trece

no hubo cosa más razonable más lógica y más sensata que la decisión del gobierno socialista de situar la formación agraria y náutico pesquera

más allá del modo en que se tomó aquella decisión en fin más allá del modo y del momento entendíamos que era lo razonable lo sensato lo lógico y lo que tenía que haberse hecho no en ese momento sino seguramente bastante antes

que lo que había antes así lo hemos defendido en alguna otra ocasión sin ir más lejos en mayo de dos mil trece cuando se debatió esta misma cuestión en la comisión

la pregunta es qué pretende el gobierno vasco qué busca qué es lo que está defendiendo qué intereses son los que está defendiendo el gobierno vasco de manera creo que incomprensible para la mayoría de los parlamentarios de esta cámara esa es la gran pregunta que nos hacemos nosotros y que se hacen muchísimos ciudadanos qué es lo que el gobierno vasco pretende qué es lo que está

nosotros compartimos la propuesta plasmada en esa transaccional en fin ya se ha dicho todos los sindicatos del sector apoyan la propuesta de estar situados en educación y todos los grupos parlamentarios excepto el partido nacionalista vasco lo vemos meridianamente claro se trata de garantizar una formación y una educación de calidad

educativa y una mejor atención del alumno una mejor coordinación y una mejor educación se trata de garantizar una óptima gestión de los centros

y se pretende también evidentemente garantizar las condiciones laborales y la estabilidad de los trabajadores de los centros se trata y es lo que se pide también en esta transaccional

con los representantes del personal de los centros públicos de formación agraria y náutico pesquera y evidentemente se trata o se pretende tener un sector público razonable y racional transparente y eficiente cosa que eso obvio

no tenemos porque efectivamente señor tellería lo que seguimos teniendo es una administración paralela creada por el partido nacionalista vasco y mantenida durante años para beneficiar a unos pocos y de esto también estamos hablando hoy evidentemente no se han dado ni de lejos los pasos necesarios para reducir

pero en todo caso nosotros seguiremos insistiendo en esta cuestión se trata de racionalizar de adelgazar esa administración paralela creada durante años por el partido nacionalista vasco mantenida también durante el gobierno socialista beneficiar a unos pocos en definitiva ya digo que votaremos a favor de la transaccional no contemplamos que haya materia tan especial

que no pueda situarse en el departamento de educación a no ser que se quiera o se pretenda seguir manteniendo determinados cotos cerrados en fin por lo tanto

que el gobierno vasco la cumpla y que impulse también todos los cambios legales que sean necesarios para dar cumplimiento a esa transaccional

señorías desde el partido popular insistimos que la formación profesional agraria y náutico pesquera es

eso creo que lo debemos de compartir todos pues si todos compartimos esto estaríamos todos de acuerdo en que esta oferta formativa sea oficial como es en este momento dentro de educación

de acuerdo en velar por una gestión transparente que sea democrática en el funcionamiento en lo económico que nunca ha sido en agricultura nunca ha sido señorías hasta ahora hasta el trabajo de los centros náuticos pesqueros

por terceros organismos qué tenemos qué queremos volver a aquello señor tellería tal vez el gobierno socialista no lo hizo de la mejora manera posible tal vez tampoco es fácil

pero fue una decisión que compartimos y que compartíamos mucho antes y que aquí en esta cámara lo hemos expresado ocasiones pero señor tellería ustedes van a conseguir hacer buenos a los anteriores en tiempo récord porque

por ser buenos gestores rápidos y ágiles podríamos no coincidir en los criterios pero

catorce meses de gobierno no sabemos si son buenos o malos no han gestionado enredan

salsean pero no gestionan manipulan con prácticas del siglo pasado y no me voy a extender en ese término

sí señor tellería y pide usted calma pues pasa la legislatura y siguen ustedes en la calma

cómo le decía tal vez la calma que pide es para descansar del trabajo de agitación que ha llevado a cabo tanto el gobierno como el partido en estos días

de los grupos de esta cámara mire es que es algo muy sencillo queremos una formación profesional agraria y náutico pesquera oficial pública no queremos chiringuitos

que es su salsa que les gusta mucho y que además lo utilizan para intereses propios partidarios y partidistas por lo tanto vamos a consentir que eso vaya adelante y si hay que modificar la ley modificaremos la ley por el interés general de la formación profesional por eso no por el interés propio

por lo tanto me parece que se han metido ustedes en una cerrazón y están a conseguir lo que tantos años han

y que les ha debido de dar muchísima rentabilidad pero es que no vamos a participar de eso no no vamos a participar por lo tanto

de haber podido firmar esta enmienda de transacción que no ha sido fácil pero que creemos que aporta algo muy importante a la formación profesional agraria

y que sea transparente limpia democrática con las mismas reglas que tiene la formación profesional en educación que nunca las han tenido en agricultura nunca las han tenido por lo tanto creo que sería bueno que recapaciten y si no está de acuerdo con todos los puntos señor tellería puede votar
aquellos que le parezcan que son correctos nada más muchas gracias eskerrik asko

sí gracias presidenta miren la mejor formación profesional no se ubica en el departamento de desarrollo económico y competitividad porque de no ser cierta esta afirmación la consejera de desarrollo económico y competitividad

estaría ya y desde hace tiempo haciéndose con las riendas de toda la formación profesional y trasladando la viceconsejería de formación profesional la dirección de formación profesional y aprendizaje

definitiva todo lo que le atañe a su departamento lo habría pasado ya

incluida porque sino qué pinta el instituto de máquina herramienta fuera de su departamento señora tapia qué pinta la formación profesional industrial fuera de su departamento qué pintan las escuelas de hostelería

dónde están en el departamento de educación como tiene que ser el ámbito competencial que según el pnv le otorga la ley de política agraria y alimentaria para tener toda la formación

es un ámbito restringido en su articulado a la materia agraria y alimentaria dónde está la competencia de formación náutico pesquera en esta ley dónde está por lo tanto mire señor tellería yo no voy a entrar al trapo de ese debate del pnv en el que usted

prisas improvisación del gobierno socialista del lehendakari lópez irregularidades

dudas razonables sospechas de que ha habido

usted conoce mejor que yo los instrumentos y mecanismos de este parlamento para solventar esas dudas y esas sospechas

vaya y denuncie vaya y denuncie pero deje de dar sospechas veladas de irregularidades en este ámbito ya está bien entre usted al fondo del asunto

ni con una serie de cuentos que no llevan a ningún sitio el caso es no entrar echar una cortina

que es por qué no están las escuelas agrarias y náutico pesqueras en el departamento de educación mire no se entiende el enrocamiento del partido nacionalista vasco en este tema

o bien se trata de que hay pequeñas miserias con estas cosas de las ambiciones en el poder cuando uno está en el gobierno por un presupuesto de nueve millónes de euros y una competencia en una materia sectorial lo que es inaceptable

es un coto de su propiedad allá donde está el tarro de las esencias de las identidades y que por lo tanto

puede entrar en ese coto nadie estamos autorizados para hablar para opinar

para determinar dónde se enfocaba la formación agraria y náutico pesquera como ocurrió el traspaso al departamento de educación eso estaba vedado

no verdad señor tellería porque si es así también inaceptable por nuestra parte yo de verdad espero que esta iniciativa que tiene hoy más consenso que se supone que van a ser cuarenta y ocho los votos que va a tener y no treinta y ocho como la que tuvo la iniciativa socialista en mayo del año dos mil trece de verdad espero que tenga un mayor recorrido y que se acepte y se respete lo que son las aprobaciones institucionales en esta cámara

porque de verdad el personal los trabajadores las trabajadoras de esas escuelas deben adscribirse

un convenio que les dé la estabilidad y el reconocimiento

de todos sus derechos yo espero que las escuelas se conviertan en centros integrados de formación donde se imparta esa formación académica del siglo veintiuno

bien formados y cualificados que vayan a impulsar el futuro del sector primario en euskadi

si los socialistas estuvimos al borde de la irregularidad con este traspaso

dos años dos cursos qué llevan ustedes haciendo

de fuerza mayor la misma que tenía el partido socialista cuando gobernaba

un diseño y un modelo de país por lo tanto esperemos que en bien de este país podamos sacar además de esta iniciativa adelante puedan ser ustedes capaces
de llevarla a efecto en el gobierno vasco muchas gracias eskerri asko

primero porque estuvo treinta y uno años y nadie la cuestionó segundo porque está en nuestro programa electoral expresamente e intentamos inicialmente cumplirlo aunque luego habrá que pactar cosas y tercero porque estamos defendiendo al sector seguramente en solitario ya pueden decir que son prácticas décimonónicas que si somos unos maniobreros yo lo único que sé es que aquí ha llegado

el clúster de la alimentación la asociación de vino abra el sindicato

la mesa intersectorial de la madera la federación de cooperativas agrarias de euskadi los centros de gestión lorra abelur y abere

las dos federaciones de cofradías de pescadores de bajura de euskadi y en álava porque no hay

eso es lo que ha llegado estos días al parlamento porque ellos así han decidido solicitando

cada uno puede sacar las conclusiones y pueden llamarle al sector idiota y que se deja manipular por alguna llamada de alguien hablen ustedes con el sector y pregúnteselo yo lo que seguiré defendiendo

insisto y al borde de la irregularidad no estoy acusando de nada estoy diciendo que se hizo mal

por cierto quiero agradecer al partido popular y en concreto a la señor lópez de ocariz el esfuerzo que ha hecho para

y yo se lo agradezco tampoco está bien que se lo agradezca mucho porque van a pensar

y además de vez en cuando tenemos que discrepar pero insisto alguien sí ha intentado llegar a acuerdos en este tema alguien se ha dado cuenta de que podríamos llegar a acuerdos no obstante seguiré manteniendo que el partido socialista no reflexionó sobre dónde estaba mejor el partido socialista se dejo llevar por presiones de los sindicatos de los trabajadores y está bien

porque incluso el once de diciembre de dos mil doce tres días antes de que el lehendakari tomara posesión

recordando los salarios que habían pactado en agosto el once de diciembre firmado por el viceconsejero de pesca y la representación sindical

lo que estoy diciendo es decir estaban ustedes más obsesionados con responder

mire la agricultura lleva mucho tiempo ya en euskadi luchando para sobrevivir es un país

necesita tener actividad agraria los costes de la no agricultura son enormes y en toda esa lucha la formación para la incorporación de jóvenes en la agricultura es imprescindible su vinculación al área agraria para nosotros es importante

solo desde el área agraria entendemos que se seguirá viendo la imprescindibilidad de la formación agraria

y no es porque educación lo haga mal sino porque se subsumiría en un sistema más grande y no quiero ser agorero pero yo juraría que en cinco años desaparecerá

alguien de mi grupo leerá este epitafio de lo que acabo de decir aquí alguien de mi grupo lo leerá vuelvo a insistir se ha hecho las cosas con urgencias

y además de que lo teníamos en el programa electoral hay una ley la de política agraria que lo dice habrá que trabajar en ese sentido mire termino con perich volviendo a lo de las prisas dios hizo el mundo en seis días hasta el momento nadie se ha podido explicar

así ha quedado como ha quedado pues eso volvamos al principio pensemos y dediquémosle todos más tiempo

siempre vamos a tener muchas gracias eskerrik asko tellería jauna mistoa upyd

objetivo de la iniciativa de upyd impedir

siga adelante con el anteproyecto que ha presentado exigir al gobierno de españa que retire el anteproyecto de ley orgánica

del modo en que lo pretende revisar la legislación vigente en españa sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo ese es el objetivo fundamental nuestro objetivo no es irnos

para impedir que este gobierno cometa un nuevo atropello el gobierno del pp vuelve a un sistema de supuestos pero no al de mil novecientos ochenta y cinco

restrictivo la malformación fetal desaparece como supuesto específico además el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la madre no es ilimitado como en mil novecientos ochenta y cinco

es decir que si por ejemplo la malformación fetal se detecta después de ese plazo la mujer ya no podrá abortar de ninguna manera salvo que la anomalía fetal sea

los requisitos para acreditar que se cumplen los supuestos legales son además más duros por lo tanto no estamos de acuerdo con este disparate y el objetivo es que el gobierno de españa guarde este disparate este anteproyecto en un cajón echar atrás este anteproyecto parar

del gobierno de españa decir que aquí tampoco estamos de acuerdo la ley de las tres erres reaccionaria regresiva

un anteproyecto que nos retrotrae a la españa en blanco y negro y nos deja en ridículo

más avanzado que deja en ridículo al gobierno de españa y al propio país y nosotros queremos cambiar

de ahí nuestra proposición no de ley donde además de incluir el rechazo contundente a este proyecto proponíamos nuestra propia propuesta una ley de plazos mejor que la actual vigente para ganar

aldaketa atzeranzko urratsa por qué esto por qué el gobierno de españa no se dedica a solucionar los problemas de los ciudadanos por qué gobierna otra vez de la mayoría social por qué toma decisiones que van en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos evidentemente las leyes pueden cambiarse pueden modernizarse pero los cambios legales tienen que ser con el objetivo de mejorar para perfeccionar la protección de las libertades individuales o para mejorar la seguridad jurídica no para hacer justo lo contrario no para llevar a cabo atropellos como el que tenemos delante este anteproyecto o pretende limitar la decisión de las mujeres embarazadas y pretende tratarlas como menores de edad que no tienen capacidad de decidir por sí mismas y deben ser tuteladas por terceros por expertos supuestamente independientes o cosa parecida

los derechos de las mujeres nos conciernen a todos ese asunto que nos incumbe a todos es cosa de todos este anteproyecto

por parte de todos los partidos políticos de la oposición supone una involución nos retrotrae al pasado nos sitúa a la cola de europa

para tapar sus recortes sus mentiras su corrupción o su incompetencia no es solo un ataque a las mujeres es una afrenta a la sociedad plural y laica porque el partido popular pretende que una ley del estado una moral particular como la moral pública que debe gobernar las decisiones personales de los ciudadanos es decir busca favorecer una moral determinada

inaceptable en fin por lo tanto y para terminar el propósito de la iniciativa es parar este anteproyecto

este anteproyecto en un cajón que escuche al conjunto de la sociedad que escuche también a este parlamento este es el objetivo parar este anteproyecto y como decía al principio no pretendemos irnos sino quedarnos para

para cambiar esas políticas y para cambiar también al propio

muchas gracias presidenta buenos días señorías volvemos a esta cámara a decir no

porque el proyecto de gallardón no es una ley antiaborto es una ley antimujer y volvemos

de que los representantes de los ciudadanos y las ciudadanas vascas ya manifestáramos con rotunda mayoría que rechazábamos las pretensiones de reforma que nos temíamos los socialistas lo veíamos venir

a laminar los servicios públicos iban a emprender el camino de laminar los derechos individuales

como bien se empeño en decir la portavoz del pp en aquel debate y como bien asumimos el resto de la cámara

que no se impulsara ninguna ley restrictiva contra el derecho de la mujer a ejercer su maternidad

es evidente que el gobierno de rajoy no nos escuchó no escuchó al parlamento vasco como no ha escuchado

como no escucha al resto de los parlamentos autonómicos ni a los ayuntamientos ni al ochenta por ciento de la población española

contra esta reforma ni al parlamento europeo ni al consejo europeo ni a estado unidos y ni escucha ni lee the times

como tampoco atiende a los profesionales de la medicina ni a los psiquiatras aquellos en los que gallardón cree que está la capacidad para decidir sobre

sordo y ciego un gobierno que solo mira hacía su derecha y que de tanto mirar hacía ese lado

a muchos de sus responsables políticos y sus votantes mientras que quienes se oponen de raíz al aborto tampoco quedarás satisfechos porque en su propia coherencia

ser contemplado pero todos los demás que he citado sin excepción entienden que la ley antimujer que propone gallardón no es ni siquiera un salto atrás de cuatro años

con la ley de plazos que ha sido seguida por la mayoría occidental y que la gran mayoría de los países europeos hoy no son cuatro atrás repito son treinta años atrás es volver

no éramos considerados como seres con capacidad para decidir sobre nuestra vida y que lo hace con vagas excusas médicas y con mentiras

cuando dice que pretende hacer que la ley que protege a las mujeres en dificultades que deseen

qué protección puede ofrecer un gobierno que directamente ha dejado sin efecto la ley de dependencia que ha recortado la gran mayoría de los servicios sociales

son medidas que ayuden a fomentar la maternidad estas esta ley no pretende ni de lejos combatir el aborto no tiene ni una sola para evitar los embarazos no deseados que es la medida más eficaz para reducir el número de abortos y miente cuando habla de recuperar el consenso del ochenta y cinco qué consenso si la entonces alianza popular votó en contra cree el ministro que el acuerdo de entonces fue bueno pues que acepte el consenso del dos mil diez

a la del ochenta y cinco así que nada de escaqueos de mentiras o falsas apelaciones al consenso el partido socialista quiere que se retire el anteproyecto citando a celia villalobos esperamos que este proyecto ni siquiera llegue a las cortes que el pp no tenga que plantearse

si debe volver a votar contra las mujeres que no se repita otra vez esta foto lamentable el otro día

del aborto con todas las mujeres del pp aplaudiendo el pistoletazo de salida de una ley que restringe el derecho de todas las mujeres por eso no aceptamos lo que propone eh bildu pensando en el día después a la aprobación de la ley no lo que queremos ahora

que este texto que está en circulación se recupere y se pase por la trituradora de los papeles que se retire

desde el gobierno y también desde la capacidad que tienen todos los representantes vascos en el congreso y el senado se haga todo lo posible para impedir que este texto se apruebe como dije en mi intervención en octubre ustedes han creado un problema

solo para complacer a los sectores más conservadores de la iglesia católica el partido socialista quiere que este parlamento comparta la defensa de la actual regulación y el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad

que supone un grave ataque a los derechos sexuales y reproductivos

y que retrotrae a nuestro país treinta años con la reforma planteada el aborto deja de ser un derecho teniendo la mujer la decisión solo

es una ley antimujeres y no antiaborto

el ya se corregirá durante su tramitación al que apela el gobierno porque el problema de la contra reforma del aborto

la cuestión es o estamos en un sistema de supuestos o estamos en un sistema de plazos o el aborto es un derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad

o es una concesión que el poder nos hace para que solo en los supuestos en los que este poder graciosamente considere se nos permita abortar

por eso los socialistas no os vamos a negociar nada porque no queremos una ley de supuestos sino de plazos que es la única que verdaderamente permite

de la mujer y en conseguir frenar este intento del pp hacemos falta todos los ciudadanos y todas las instituciones que estemos convencidos

hay un solo conflicto el del pp con sus votantes quienes consideramos que la mujer debe tener garantizado su derecho a una maternidad

sin tutelas defenderemos la actual ley la que no ha creado problemas porque ha reconocido a la mujer como un ser responsable por eso votaré a favor de la enmienda transaccional

que hemos firmado y que vamos a votar la mayoría de la cámara como ocurrió también en octubre porque además esta enmienda transaccional recoge lo que ya recogía

la retirada inmediata del proyecto así como también que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a ponerse activamente mediante todos los medios legales necesarios

dentro de nuestro marco competencial sean necesarias para garantizar el derecho

libre y responsable como puede ser en su día presentar el recurso

porque creo que en la defensa de los derechos de la mujer

nahi ez diren haurdunaldiak saihesteko eta ondorioz etenaldi posibleak saihesteko decíamos que el voto favorable a la hora de aprobar la ley vigente no era sinónimo de apoyar el aborto como solución en un aspecto tan controvertido como este en el que las delimitaciones son tan difusas lo mínimo que podemos hacer no imponer un código ético y moral a quien no comparte ese código y legislar para todos el pnv siempre va a considerar el aborto como el resultado de un fracaso pero es una realidad que las interrupciones del embarazo se producen cada día

estas interrupciones deben darse bajo una seguridad médica y jurídica que la ley actual garantiza una ley que integra la objeción de conciencia médica y que ataca la causa de origen mediante la prevención y la información y así evitar los embarazos no deseados

existen datos estadísticos reales no es ninguna invención que desde que la ley actual está vigente se producen menos abortos etxeberria andreak

señor maneiro nos sale nuevamente con la idea de ampliar el plazo legal de las catorce semanas para la interrupción del embarazo que es lo que su partido planteaba en la proposición no de ley que hoy debatimos hemos llegado a un consenso amplio hoy entre todos los grupos excepto el grupo popular durante las negociaciones no mencionaba el tema

ha salido con el tema ahora otra vez durante su intervención

me resulta un tanto extraño que su partido político que tiene algo más de representatividad y fuerza en las cortes de madrid no mencione este tema de los plazos al menos de hecho en las últimas iniciativas en las cortes relativas al proyecto de reforma de ley del aborto la moción urgente planteada por la izquierda plural

por el psoe ambas iniciativas su partido las apoya y no mencionan nada acerca de los plazos en cambio aquí con un único representante nos presenta la proposición planteando un cambio de los plazos legales establecidos para practicar el aborto pues hombre se nos hace un poco

pero en este caso no se trata de eso se trata de evitar que la reformen completamente y que se cree un grave retroceso en esta sociedad y no entrar a cuestionar cambios sustanciales

a la hora de establecer ese plazo legal de las catorce semanas y que además es un plazo como el que está establecido en la mayoría de los países europeos por lo que entendemos

ese cambio bukatzeko esan erdibideko

bien voy a intentar llevar un debate sosegado porque creo que ni por gritar

y muchos adjetivos como se han hecho aquí se tiene

nos encontramos debatiendo una vez más en esta cámara y como en otras ocasiones una iniciativa legal que todavía no ha

porque ustedes señorías todos ustedes lo que están solicitando es que no se debata

es un anteproyecto y que en nuestro entramado institucional que tiene competencia para abordarlo es el congreso de los diputados como decía lo que existe en este momento es un anteproyecto que ha iniciado su andadura se dice que no se escucha a nadie ahora es cuando se va a escuchar ha iniciado su andadura este anteproyecto su tramitación y será informado por distintos órganos consultivos como el consejo de estado el consejo general del poder judicial el comité de bioética el colegio de médicos colegio de enfermería

consejo nacional de la discapacidad asociaciones de mujeres comunidades autónomas etcétera y podrá ser con el concurso de estos informes objeto de debate de mejora de nuevas aportaciones y de diversos enfoques como en el resto de los anteproyectos

de ministros y su remisión a los órganos consultivos llegará a las cortes generales para en ese momento dialogar debatir analizar posiciones y sugerencias

pero ustedes lo que pretenden es privar al ejecutivo al gobierno de su capacidad de iniciativa y al legislativo al congreso de los diputados de su trabajo parlamentario todavía como decía no ha comenzado el trabajo parlamentario y ustedes ya están pidiendo la retirada como se les ha dicho en los múltiples debates del congreso de los diputados

porque la suya es la política de la oposición por la derogación eso sí

socialista es el único que está legitimado para derogar y reformar todo lo que no nace del trabajo del partido socialista parece que hay

y nadie puede plantear ni su reforma ni su derogación el gobierno del partido popular quiere reformar la ley del dos mil diez sí sí claramente

era una reforma anunciada y además es una reforma coherente y consecuente es coherente y consecuente con la postura que siempre ha mantenido el partido popular de conciliar la protección de dos bienes jurídicos dos bienes jurídicos algo que ninguno de ustedes ha mencionado

con la postura mantenida durante la tramitación de la anterior ley donde presentamos una enmienda de totalidad a la misma un veto en el senado establecimos un voto particular

y por último es coherente y consecuente con lo recogido en nuestro programa electoral tal y como dije aquí en octubre del año pasado la reforma supone sí volver a la ley de supuestos como en el año mil novecientos ochenta y cinco supone no criminalizar a la mujer eliminando todas las penas

de que las menores de dieciocho años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres

más allá de poner de manifiesto que la necesidad de la reforma viene justificada porque la ley ahí lo deja totalmente desprotegido uno de los dos bienes jurídicos el del no nacido porque la protección del bien jurídico del no nacido

es una obligación que establece la constitución sí señor maneiro la constitución no la moral la constitución y así lo ha reconocido el tribunal constitucional

por ello una ley de plazos implica una situación de desprotección absoluta que es incompatible con nuestra constitución es preciso hacer una consideración previa en torno a la iniciativa legislativa en curso y el doble rasero que en numerosas ocasiones se utiliza

se realiza la reforma que ni se llevaba en el programa electoral ni existía una demanda social porque no existía ni se planteó por el propio gobierno se hizo esa reforma sin ninguna gerencia externa

cuando lo pretende hacer el gobierno del partido popular siendo consecuentes y coherentes con su posición siempre mantenida y con el programa electoral votado mayoritariamente por mandatos e injerencias ajenas y se le niega la legitimidad para hacerlo y también hay que negar dos afirmaciones que no se cansan de repetir y que son absolutamente inciertas

no es cierto no se engañen el consenso lo rompió el gobierno socialista un consenso mantenido durante más de veinticinco años desde el año mil novecientos ochenta y cinco con gobiernos del partido socialista y gobiernos del partido popular uno de ellos con mayoría absoluta pero que no modificó esa ley del mil novecientos ochenta y cinco como he dicho cuando no lo había incluido en su programa electoral cuando no formaba parte de los compromisos adquiridos en el debate de investidura pasado ya ampliamente el ecuador de la legislatura y emprendiendo una reforma legislativa del aborto respondiendo a una demanda política porque no existía una demanda social no

solo un año antes que no existía esa demanda social lo que se pretende como les decía es volver al consenso a una regulación ajustada con la normativa constitucional que contemple los dos derechos los de la madre y los del no nacido porque los dos existen

y se pretende como decía volver a esa conciliación de la protección de los derechos en una ley de supuestos o indicaciones que apoya la mayoría y segundo

no tiene en cuenta los derechos de la mujer que es una ley contra la mujer eso no es cierto

eso no lo va a convertir en verdad ni la ley aído daba derechos a la mujer ni la ley que en este momento está en trámite se los quita claro que tiene en cuenta los derechos de la mujer pero como le digo sus derechos no son absolutos no son ilimitados existen

armonizados y cuando no es posible hacerlo se deben precisar las condiciones y los requisitos en los que se dé la prevalencia de uno de ellos y no lo dice solo el partido popular lo dije aquí hace cuatro meses en otros grupos políticos esto también se pone de manifiesto el propio tribunal constitucional al señalar

lo dijo el informe del consejo fiscal a la anterior ley y eso es lo que recogía

señorías hasta en el propio título se quiere recoger esto mientras la ley aído se denominaba ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

del concebido y de los derechos de la embarazada la ley del dos mil diez presenta el aborto como un derecho aunque en algunas iniciativas hablan de derecho a decidir hablan de derecho a una maternidad

el pretendido derecho al aborto no existe en nuestra legislación ni en ninguna normativa internacional no aparece en los textos internacionales firmados por españa ni en el convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de mil novecientos cincuenta

no existe un derecho al aborto así lo dictaminó el consejo de estado cuando informó

lo dejó claro el parlamento europeo el diez de diciembre del año pasado y con anterioridad

por ellos señorías lo que procede es el debate

es empezar entre todos a debatir y hay que poner de manifiesto y se ha dicho aquí que el aborto puede tener consecuencias graves para la mujer y así está establecido médicamente

no es una solución como algunos lo presentan sino un fracaso político y un fracaso social un fracaso de las políticas de prevención de embarazos no deseados

por eso es necesario plantearse una reforma de la ley vigente permitan ustedes que la ley llegue a la cámara señorías si tan seguros están de sus argumentaciones sometan las mismas a debate aunque es verdad que a ustedes sobre todo a ustedes señora sánchez y los socialistas lo de debatir no les gusta la subcomisión en la que se debatió la ley de dos mil diez debía durar al menos

semanas sin comparecencias de los ministros de igualdad y de justicia y por qué le dieron carpetazo pues porque muchos de los comparecientes no eran proclives a sus tesis

y ahora quieren hacer lo mismo quieren impedir el debate y para ello son capaces de poner en duda la legitimidad del gobierno mayoritariamente elegido

como decía solo la izquierda puede reformar las leyes en este país porque como también dije aquí y quiero reiterar creen gozar de una superioridad intelectual

las mujeres del partido socialista solo su opinión vale y en cambio las mujeres la opinión de las mujeres del partido popular esas que usted ha enseñado en una foto no vale porque las opiniones de o de mujeres solo valen si coinciden con las suyas y ahora pretenden negar como decía legitimidad al gobierno de partido popular para reformarla que a quién hemos preguntado

y lo votaron mayoritariamente mayoritariamente qué sucede

lo que sucede aquí es la única opinión

eso no cuenta señorías finalizo ya es necesario escuchar y debatir ayer mismo ayer mismo

porque el consenso significa acordar y ustedes

porque lo digo yo y lo que digo yo y todo lo que no es lo que digo yo y porque lo digo yo ya está mal es necesario escuchar y debatir y nosotros lo que queremos es escuchar y debatir señorías no tengan miedo al debate
llanos andrea no destierren el debate dejen ustedes que se haga eskerrik asko llanos andrea